biktimaren senideei eta urrekoei el parlamento vasco condena dicha muerte así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave

derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres eusko legebiltzarrak herritarrei eskatzen die

presento esta moción en nombre del grupo popular a consecuencia de la interpelación que el día siete presentábamos a la señora consejera referente a los propósitos que tiene el gobierno para apoyar la promoción y la comercialización de la producción ecológica

la producción ecológica no figuraba ni en los presupuestos ni en la memoria de los presupuestos ni en los planes que el gobierno planteó para esta legislatura por lo tanto

nos invitó a presentar la interpelación nos alegramos que la señora consejera nos dijera que efectivamente tenían intención de trabajar en la promoción de la agricultura ecológica y por lo tanto

porque la coincidencia yo creo es bastante general y desde el grupo popular en

y que si en el resto de españa ha experimentado un importante auge no ocurre igual en el país vasco

por las que la producción ecológica no termina de repuntar en el país vasco son diversos los factores que influyen como decíamos en la interpelación no los voy a repetir todos pero

claramente si bien el sector productor ha ido evolucionando hacía una profesionalización de sus estructuras productivas de su manera de este tipo de producción y esto se ve claramente en la evolución que han tenido sus productos el volumen de las producciones la calidad el aspecto y la presencia luego manifiestan dificultades importantes para avanzar

añadido a su producto carencias en estructuras permanentes para agrupar y acondicionar el producto para la comercialización además de estructuras de transformación está claro que existe una demanda de producto ecológico en el país vasco
la demanda supera la oferta y no tenemos productos isiltasuna mesedez

ecológico para satisfacer la demanda que existe en la comunidad autónoma la demanda de ese consumidor que principalmente busca una alimentación más

como decía en la interpelación hacíamos referencia a algunas de las medidas que son necesarias para fortalecer la producción ecológica principalmente

que responden mejor a la producción en nuestra tierra y en nuestro ámbito equipamientos necesarios para la comercialización

comercialización nos reclamaban los productores una coordinación institucional

la producción ecológica hay algunos aspectos que

diputaciones forales y otros que dependen del gobierno y por lo tanto la coordinación es fundamental y por eso decíamos que es necesario un eje vertebrador un plan ya no le décimos al gobierno cómo lo tiene que llamar pero sí un eje vertebrador en el que vayan engarzando todas las medidas de manera que exista esa coordinación y demos una fortaleza a la producción ecológica que es en definitiva lo que nos están pidiendo

nos parece un sector importante porque diversifica la producción tradicional

y los productores nos decían que había gente que se había sumado a hacer producción ecológica y que lo había dejado

porque eso es una frustración importante para aquellos que en un momento han tenido la intención o han tenido esa impronta de

deben establecer medidas para fortalecer el sector de producción ecológica por eso presentamos la moción que fundamentalmente dice que en el plazo de tres meses el gobierno presente una estrategia para el apoyo a la producción ecológica en el país vasco en coordinación con las administraciones competentes y organizaciones sectoriales

apoyar la evolución y consolidación de la producción ecológica

de productos ecológicos y reforzar la vertebración sectorial que se haga visible en los estudios y estadísticas de agricultura y ganadería

igualdad de condiciones que el resto de producciones agrarias que dicha estrategia vaya acompañada de un sistema de seguimiento y evaluación de las diferentes líneas de apoyo programadas y se informe de los resultados obtenidos bianualmente que

en este año contemple una línea específica de apoyo a los productores de agricultura ecológica decir que a esta moción se ha presentado

socialista de adición que están recogidas que son el punto seis y siete y que la señora corcuera seguro los explicará en su intervención y luego el señor lazarobaster portavoz de bildu ha presentado

líneas de actuación que entendemos que de alguna manera están recogidas en el punto dos y en los puntos de nuestra moción y

que están recogidas ya en el texto de enmienda de transacción que se va a poner a votar

upyd va a poyar esta iniciativa pero le invitaría apoyarla porque entendemos que es además de que coincidimos todos y tiene un amplio consenso nos gustaría que

de esta cámara porque entendemos que así nos lo plantearon los productores el apoyo que ellos les gustaría tener por lo tanto

mil novecientos ochenta y ocho se dio en españa el primer paso para dar carta de naturaleza jurídica al método de producción ecológica cuando se reguló por real decreto

a la decisión de la unión europea que en mil novecientos noventa y uno publicó

en el año dos mil cuatro el ministerio de elena espinosa pone en marcha el primer plan estratégico para la producción ecológica en españa y después

elabora y ejecuta el segundo plan integral de actuaciones para el fomento de la agricultura ecológica en españa para el periodo dos mil siete hasta dos mil diez hace unos día se ha presentado en madrid la estrategia para el apoyo a la producción ecológica

y un plan de acción sobre la agricultura ecológica así pues desde mil novecientos ochenta y ocho estamos asistiendo

respecto a la producción ecológica más que estimable y que tiene además correspondencia directa con la evolución positiva que la agricultura ecológica

y que se ha concretado en un fuerte incremento tanto de la superficie que se dedica a esta forma de producción como el crecimiento del número de operadores tanto agrícolas como ganaderos y el crecimiento en la elaboración y comercialización de estos productos que ha derivado en un hecho

la producción ecológica se mueve en unas cifras francamente abrumadoras en el mundo hay treinta y siete millónes y medio de hectáreas destinadas a la agricultura ecológica que ocupan a un millón ochocientos mil productores y proporcionan materia prima

el mercado mundial de estos productos se sitúa en sesenta y seis mil quinientos millónes

y en este contexto españa se sitúa como quinto país del mundo y primero de la unión europea en cuanto a superficie destinada a la producción ecológica aunque en cuota de mercado estamos en el décimo puesto por lo tanto hay todavía un margen más que potencial para el crecimiento

si nos centramos en euskadi tal y como decía antes el señor lazarobaster

el nivel de implantación de este modelo de producción es aun más que modesto porque solo el uno coma siete por ciento de la superficie agraria se trabaja en lo que comúnmente conocemos como ecológico en los últimos cuatro años en euskadi en el país vasco el número de personas que trabajan en este modelo de producción se ha incrementado un sesenta por ciento

de euskadi que hay trescientos ochenta y nueve operadores y empresas cuatrocientos setenta y cuatro censos productivos y que la superficie agraria inscrita es de dos mil seiscientos veintisiete hectáreas la tasa de crecimiento

en el último año bien pero más allá de los datos numéricos o porcentuales que demuestran que en euskadi la producción

mucha senda mucho recorrido por delante es constatable que en el país vasco

hay un buen clima una buena sintonía que tiene además este modelo de producción muy buena prensa y que debemos además ponerlo en valor entre todos e impulsarlo porque la producción ecológica es el modelo ahora mismo que provoca un mayor interés entre las personas jóvenes que se acercan a lo que es el sector agrario y que aún en los peores años de esta crisis económica hemos visto y vemos

está creciendo la producción ecológica es un sector económico sin duda

con mucho atractivo también para los ámbitos formativos como las escuelas agrarias que así lo han venido demandando cuenta además a su favor con un alto grado de profesionalización con un importante compromiso y garantías de transparencia por parte de las personas y empresas que se dedican a la agricultura ecológica y que además incide

en la confianza del consumidor estamos hablando de un sector plural y diverso implantado en los tres territorios con más de quinientos productos agrarios certificados y que se caracteriza por pequeños productores y elaboradores con métodos de producción artesanos que atienden un mercado de proximidad de venta directa a grupos de consumo

por tanto un sector que representa una oferta de calidad nutritiva organoléptica y medioambiental realmente excepcional y estamos ante una producción que se basa en principios y compromisos de transparencia de información de evaluación de mejora continua y que ofrece además muchas garantías al consumidor

basándose en los principios de protección a la salud de los suelos a los ecosistemas y cómo no a las personas

a este tipo de agricultura así que en todos estos aspectos que son todos ellos positivos que envuelven a lo que es la producción la agricultura ecológica biológica u orgánica

existen problemas que hay necesidades y que de verse solventadas estas

y es por ello que estando básicamente de acuerdo con la iniciativa presentada los socialistas

por un lado que la consejera de desarrollo económico y competitividad manifestó el pasado siete de marzo

con también de la mano de las diputaciones forales y con el resto de administraciones territoriales así como con otros agentes sectoriales al ser la producción ecológica un objetivo prioritario en la programación del próximo plan de desarrollo rural y considerando que está bien que se haga un plan también nos parece aun mucho más adecuado que se ponga un plazo para su elaboración

de unas líneas estratégicas que se vayan a ejecutar y de las actuaciones y medidas específicas que van a desarrollar esas líneas estratégicas

que ese plan y sus medidas puedan evaluarse en cuanto a su eficacia en cuanto a sus resultados y que puedan además adecuarse esas líneas y medidas y adaptarse ante nuevas circunstancias

eficaces los representantesdel consejo de agricultura y alimentación ecológica nos expusieron su realidad los desafíos actuales de la agricultura ecológica

unos recursos económicos estables para evitar por ejemplo que se redujeran el número de analíticas por falta de subvención o por falta de una estabilidad presupuestaria

clara en la divulgación del mensaje sobre alimentos ecológicos locales

que es algo que habitualmente se venía haciendo necesidades de establecimiento de políticas de discriminación positiva en el ámbito ecológico necesidad de dejar de ser marginales una producción minoritaria y fundamentalmente una necesidad de planes de acción y de indicadores para evaluar los resultados

esas necesidades que quedaban o poco explicitadas en la iniciativa o que podían resultar algo ambiguas por eso hemos propuesto la adición de los recursos económicos estables y el esfuerzo en la divulgación y en la comunicación sobre la producción ecológica por parte de las administraciones nos parecía importante y sustancial y es algo que también

tienen mucha tarea por delante para el impulso y promoción de este tipo de producción es decir de la alimentación

para que realmente este sector sea relevante en lo que es el ámbito agrícola vasco también creo que las entidades que están implicadas en este tipo de producción

en lo que respecta a establecer exclusivamente circuitos cortos de comercialización los consumidores estamos cambiando de hábitos de consumo

la diversidad de productos pero también ser cómplices y parte activa en un desarrollo medioambientalmente sostenible

la agricultura ecológica y los consumidores tenemos mucho que decir y mucho por hacer yo creo que coincidimos realmente en el análisis sobre la producción ecológica y que no estamos tan lejos de conseguir aunar consensos en cuanto a las medidas a promover

porque no se satisfacen determinadas cuestiones no se ha podido llegar a una unanimidad en lo que

no estamos de verdad no hay tanta diferencia entre lo que propone la enmienda transaccional el grupo enmendante de bildu pretendía con su enmienda entre el todo y nada hay un camino medio hay una posición media que creo que es la importante y creo que hoy se va a dar y es que haya un plan para la producción

egun on guztioi estamos ante otro asunto agrario de importancia

de importancia relativa nolanahi ere garrantzitsua da

urrun también es cierto que en los últimos cinco años el consumo de productos de agricultura y ganadería ecológica en europa se ha estancado las razones son complejas no voy a entrar en ellas pero en cualquier caso en euskadi tenemos mucho trabajo por delante para llegar siquiera

que el sector se ha movido con lentitud lo que ha venido probablemente motivado por una cierta prioridad sectorial hacia una actitud social más que por la búsqueda de nuevos nichos de mercado

la agricultura ecológica como otro tipo de sectores o producciones agrarias

como un modo de ser o pertenecer a la sociedad incluso puede plantearse como una actitud reivindicativa lo que resulta absolutamente respetable no obstante y a las cifras me remito no ha sido suficiente para movilizar un sector que sin lugar a dudas en una sociedad moderna avanzada y sensibilizada como la vasca debería tener una cabida más digna

una planificación estratégica que ubique la agricultura ecológica en el lugar que le corresponde con visión de estructuración sectorial apoyando la creación de empresas con visión de mercado

no me resisto a efectuar un pequeño análisis del modo en que hemos llegado aquí otsailaren hogeita zortzian euskadiko produkzio ekologikoko kontseilua etorri zen

la señora lópez de ocariz comunicó que iba a presentar una interpelación sobre el tema a la consejera del ramo dicho y hecho el día siete de marzo se sustanció la interpelación y transcribo aquí o leo aquí alguna frase la consejera arantza tapia expresó al principio de su comparecencia lo siguiente empezó así

como ven para empezar compartían hasta los datos a continuación señaló en la actualidad

para poder hacer frente a esta situación y ponernos en los ámbitos en los números y en las cuotas en los que queremos estar continuaba queremos trabajar y estamos trabajando en la redacción

con el resto de administraciones con las diputaciones forales y con otros agentes sectoriales en establecer un modelo de producción con marcado carácter prioritario

y cuando tengamos un primer borrador desde luego lo compartiremos con todos los grupos del parlamento e iremos mejorándolo para que nos permitan tener un desarrollo futuro garantizado

uno y dos de su propuesta y parte del cinco quedaban resueltos pero intervino usted y de nuevo la señora consejera que entre otras cosas dijo no puedo estar más de acuerdo en lo que dice había una sintonía extraordinaria y dijo recojo el guante en lo que me dice de que la agricultura ecológica tiene que estar en la estadística estoy de acuerdo su punto tres

porque creemos que lo tenemos que hacer porque creemos que es un eje importante punto cinco

y más en cuanto a elaboración del plan estratégico sabe usted que precisamente soy un poco maniática con el tema

evidentemente llevará su evaluación y su metodología de mejora no tengo la más

con esto que dijo la señora consejera el punto cuatro de su propuesta quedaba apuntalado

habló de más cosas como tenemos que divulgar la marca y tenemos que divulgar la cultura que también asume su propuesta en los añadidos transaccionados con el partido socialista

en cuanto al consejo de agricultura ecológica pues dijo la consejera aquello de apoyar al propio consejo de agricultura ecológica en todas sus funciones porque creemos que es un ámbito en el que se aglutinan todos los productores o la mayoría y puede servir además de referencia

luego ya está el presupuesto al que por cierto tanto partido socialista como partido popular ayudaron a aprobar y que para el año dos mil catorce solo para el consejo de doscientos veinte mil euros suponemos que de momento pueda ser suficiente

espero que también el presupuesto pues bien si ante su interpelación la consejera le contestó a todo lo que usted pretende que el gobierno haga que sí que lo va a hacer

por eso nuestro voto va a ser no puede haber otra posibilidad que sí a toda su propuesta a la transaccionada

que la proponga usted que también porque forma parte de nuestras intenciones y porque el gobierno ya lo está abordando

lo que la coloca en el primer plano de la información pública y traslada

unánime pero de ahí a traer una obviedad pedirle al gobierno que haga lo que el gobierno ha dicho que está haciendo pues bueno parece un pelín

en cualquier caso bienvenido sea hablar de la agricultura ecológica hoy minoritaria

no solo porque el gobierno se empeñe sino porque también el sector asuma sus propios retos de profesionalización el despegue desde nuestro punto de vista podría ser

de siembra un acto y cosecharas un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter

así debe plantearse este plan estratégico lo de hoy por obvio y porque pedimos hacer lo que ya se está haciendo más que moción

se empeña en incidir en algunos aspectos de la interpelación y de lo que la consejera dijo que estaba haciendo yo me voy a remitir

y en ese plan en ese documento lo que nos dice es objetivos apoyo al sector productor

mejora de la gobernanza desarrollo del sector productor pesquero y fomento de la acuicultura punto ocho puntos la agricultura ecológica

es que a mí me sorprende primero que el gobierno esté haciendo aquello que dijo o no dijo que iba a hacer y que lo que pone aquí que iba a hacer no lo está haciendo

esté trabajando o diga que está trabajando en un plan de la producción ecológica me parece importante y me voy a centrar ahí también tengo que decirle que a las diputaciones todavía no les han llegado ninguna información de esto

pero yo no voy a poner en duda la actitud del gobierno voy a creer en la señora consejera

y así y todo resultará muchísimo más fácil por lo tanto

que la enmienda de transacción va a salir apoyada mayoritariamente y por lo tanto no va a poder votar su enmienda

a dicho que usted se va a quedar con la votación de su enmienda no la va a poder votar y yo le animo de verdad

porque recoge lo que usted ha dicho aquí y además por si tiene alguna duda si en el primer punto décimos que ese plan esa estrategia se haga gobierno vasco diputaciones y los representantes del sector

y muchas más cosas claro pero dejará usted alguna impronta al sector para que lleve a ese grupo de trabajo para desarrollar el plan por lo tanto

es que discrepancia no tiene ninguna nada más muchas gracias eskerrik asko

con su permiso desde el escaño para

dos cuestiones por un lado hombre negarse negarse o plantearse que traer aquí

como una iniciativa porque el consejero o la consejera de turno ha mostrado su acuerdo ante una interpelación

además de para una producción legislativa para el impulso y control de la acción de gobierno y esta moción es una iniciativa que va en ese sentido no hay por qué creer a fe ciega lo que un consejero o consejera nos dice en una respuesta a una interpelación sino que hay que impulsar y promover que esas acciones que nos dice que pretende llevar a cabo pues se cumplan y con unas determinadas condiciones que es lo que se ha pretendido hacer a través de esta iniciativa y de este consenso

en primer lugar que vamos por partes el grupo socialista ningún vértigo a ese cambio en el sistema

creo que los hábitos de consumo están cambiando que los consumidores vamos hacia una alimentación mucho más saludable creo que además la producción ecológica va en ese sentido respetando además una serie de principios que compartimos y además no hay ningún problema porque el grupo socialista

me consta además que hemos promovido el hecho de que la producción ecológica y la alimentación ecológica llegue a los pliegos de condiciones de los comedores de residencias

y de centros públicos regidos por esas instituciones por lo tanto ningún vértigo en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer aquí hoy y

del grupo bildu es que hace falta un plan no sé si tiene que ser un plan integral o un plan estratégico pero que hace falta un plan

la solución para las necesidades que nos planteó el consejo de alimentación ecológica de euskadi me parece también acertado y creo que estas medidas contemplan esa posibilidad hombre es difícil plantear en una enmienda transaccional

francamente imposible pero creo que esta enmienda que hoy hemos consensuado esta iniciativa creo que va por esa senda y que va por buena senda otra cosa es que podamos exigir más o menos

por eso me alegro de que el tema de la producción ecológica pueda encontrar hoy sentido y reflejo a lo que nos plantearon desde el consejo

ecológica y creo que todavía queda mucho mucho camino por hacer esperemos que el primer paso haya sido el bueno y el favorable y el definitivo gracias eskerrik asko

ni yo tengo fe ciega en los consejeros tengo fe en

lo único que he venido a decir es que las mociones son consecuencia de interpelación y en la moción la consejera ya dijo una serie de cosas que iba a hacer y yo entiendo que es un compromiso público delante de esta cámara de que lo va a hacer pero previamente una semana antes el consejo de agricultura ecológica nos dijo exactamente lo mismo que estaban trabajando juntos en un plan pues

a la enmienda de transacción otra cosas es que es una obviedad y vuelvo a insistir es

porque por cierto sí no estaba en los planes en el catálogo de planes señora lópez de ocariz pero en el programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis

una iniciativa de fomento de la agricultura ecológica otra cosa es que digamos que es un plan sobrevenido eso también ocurre cuando el sector va al gobierno y le dice oiga ese fomento lo convirtamos en plan pues lo convierten en plan viene el sector y dice vamos a hacer un plan con el gobierno viene el gobierno y dice vamos a hacer un plan con el sector

que hagan ustedes juntos un plan perfecto ya estamos todos de acuerdo pero es una redundancia sin más y yo mire

seguramente de esta cámara seré el que más ha sufrido del aparato digestivo desde los veinte años y jamás

comer producto ecológico me han recomendado no comer grasas no comer basura y seguramente por eso estoy estropeado por eso y por eso me he quedado pequeñito seguramente pero

y ya lo he dicho yo el producto ecológico es medioambientalmente mucho más razonable y saludablemente mucho más saludable en calidad

no voy a decir yo que es peor de calidad el producto ecológico habrá de todo buena y mala calidad

usted que tiene tanta obsesión con kalitatea en todos los catálogos de kalitatea sale el producto ecológico en todos los catálogos de kalitatea sale el producto ecológico

no tengo vertido a debatir el problema de su enmienda es que es muy similar a la transaccionada eso es verdad pero usted hace el guión del plan pide que se haga un plan pero les hace el guión

que hagan el guión y además el gobierno se ha comprometido a traerlo aquí para debatirlo debatamos con el gobierno

pero déjele que lo haga y no marquen un guión cómo tiene que ser

la prioridad de las políticas públicas en la agricultura ecológica por qué debatamos por qué pero en el plan no antes

que lo va a hacer el sector ha dicho que lo va a hacer junto con el gobierno démosles un tiempo nos han prometido que van a venir y cuando vengan
sentiremos vértigo o amistad o lo que nos dé la gana muchas gracias eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señora

unos días una interpelación en relación al plan de euskera que se quiere poner en marcha en e i te be

y de los argumentos planteados por la consejera nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una moción que es la que presentamos en el debate de hoy esta moción lo que planteaba era que este parlamento instara a la dirección de e i te be a retirar el plan de acción dos mil trece dos mil dieciséis en el que se establece los perfiles de euskera obligatorios para todo el personal al servicio del ente

subcontratadas de forma especial proponemos que este parlamento inste al ente público

sus emisiones exclusivamente en castellano como radio euskadi y radio vitoria y proponemos que este parlamento pida a e i te be a que

no vaya a ser imprescindible para el correcto desarrollo del trabajo que debe desarrollarse creo que el plan lo conocemos todos las posiciones están fijadas sabemos perfectamente de qué

sabemos cuáles son los objetivos del gobierno sabemos cada uno de nosotros cuáles son los objetivos o las prioridades que nos marcamos en relación a esta cuestión

en fin creo que no merece la pena que analicemos aquí expresamente qué es lo que dice este plan aunque sí cabe recordar y señalar que e i te be no nos presenta un plan para su racionalización o para su redimensionamiento

un plan para hacerla viable para hacerla eficiente para hacerla sostenible

e i te be no nos presenta un plan para mejorar la calidad de su programación o para mejorar su profesionalización o para mejorar su profesionalidad

asegurar su neutralidad informativa o su pluralidad tampoco nos presenta e i te be un plan para mejorar sus índices de audiencia y tampoco evidentemente e i te be nos presenta un plan para dejar de ser un instrumento al servicio del nacionalismo que es lo que básicamente ha sido

durante estos meses de legislatura como varios grupos por activa y por pasiva hemos denunciado durante los últimos tiempos no nos presenta un plan para alcanzar

a los que en nuestra opinión se debería enfrentar e i te be nos presenta un plan para la imposición lingüística

que está fuera de lugar y por eso nosotros proponemos proponíamos y proponemos más allá de que pueda haber una transaccional quizás a la que se sume el partido socialista

el rechazo de este plan ya digo que cabría la posibilidad de firmar con el partido socialista también además de con el pp una transaccional para pedir gobierno para pedir a e i te be la reformulación de este plan a la espera de que es lo que nos diga el grupo socialista nosotros en principio

transaccional que hemos firmado con el partido popular y que luego explicaré ya digo que el plan lo conocemos ahí se señalan sus líneas estratégicas

acciones en fin podemos decir que algunos objetivos son razonables podemos decir también que algunas acciones que se plantean son comprensibles son entendibles

apoyadas por una mayoría parlamentaria pueden ser defendidas por todos los grupos de la cámara algunas líneas estratégicas quizás

algunas acciones pero lo cierto es que en lo fundamental nosotros no podemos estar de acuerdo y es especialmente en la imposición de determinados perfiles lingüísticos para determinados puestos de trabajo donde esos perfiles lingüísticos no son en absoluto necesarios para realizar perfectamente su labor hay temas anecdóticos

en este plan en fin las clásicas obsesiones de algunos en relación con la política lingüística y en relación con el euskera se introduce la figura del tutor lingüístico se dice se organizarán parejas tutor pupilo para que

en euskera se establece un protocolo de bienvenida para los nuevos para darles a conocer que en e i te be se ha apostado por el euskera no se establece un protocolo para explicarles que en e i te be se garantiza la mejor calidad posible

se establece la neutralidad informativa no se establece un protocolo para dar la bienvenida a los nuevos y decirles que e i te be ha apostado por el euskera hacia el exterior la primera relación se hará en euskera etcétera en fin muchas acciones que van en esta línea nosotros en todo caso no consideramos en absoluto prioritarias pero lo importante es el asunto de los perfiles lingüísticos lo importante y lo que nosotros rechazamos de manera contundente es la pretensión de imponer determinados perfiles lingüísticos a los trabajadores del ente es evidente que el euskera no todos lo necesitan para realizar correctamente su trabajo se establece el nivel ce uno en general para todas las categorías se establece el nivel ce dos para periodistas y lingüistas se estable el nivel be dos para los puestos que no son centrales en e i te be

que acreditaron al entrar pero no podrán acceder a promoción interna si no coincide su nivel con el exigido

los trabajadores en bolsa de trabajo tienen de plazo hasta la renovación de la bolsa para acreditar el perfil lingüístico a los becarios y estudiantes en prácticas se les exige el perfil

en las oposiciones será necesario acreditar el perfil para continuar el proceso de selección en los contratos exteriores cuando el servicio haya de ofrecerse en las sedes de e i te be se les exigirá por contrato que sus trabajadores cumplan el perfil lingüístico en fin

en absoluto nosotros tenemos claro cuáles son los objetivos cuáles son los retos de la e i te be

opinión los objetivos y los retos de e i te be

mejorar la calidad mejorar el servicio público que se ofrece ganar audiencia aunque sea un servicio público

siempre es un objetivo tratar de ganar la máxima audiencia posible mejorar la profesionalidad

y de sus trabajadores asegurar su neutralidad informativa estos son los objetivos que debería plantearse prioritariamente e i te be

la política lingüística y machacar a los trabajadores del ente cuando no es en absoluto necesario creo que e i te be debería hacer frente a los grandes problemas que tiene en la actualidad

en general siempre se ha comportado de una forma sectaria a favor de los intereses del nacionalismo pero especialmente

corregir que deje de ser un instrumento al servicio del nacionalismo para convertirse en un servicio público al conjunto de la sociedad estos son los grandes retos estos son los grandes problemas que debe corregir

e i te be y sus objetivos son dar una imagen de calidad de profesionalidad de neutralidad informativa de servicio público de pluralidad

una imagen euskaldún como se señala sino sobre todo una imagen de calidad

mayoritariamente la ciudadanía vasca opta por escuchar la radio y ver y escuchar la televisión pública en castellano ahí están las audiencias es un hecho y por lo tanto nos parece un exceso

que a todos los trabajadores del ente se les exijan conocimientos en euskera está fuera de lugar y está fuera de lo que realmente necesita el ente para el mejor servicio público posible de ahí nuestra moción tengo que decir que la enmienda de totalidad del grupo popular

correcta de sentido común y también lo que plantea el grupo socialista en su enmienda nosotros hemos o estamos a punto de firmar una transaccional con el grupo popular que diría lo siguiente el parlamento vasco insta a la dirección de e i te be a retirar

hasta que se realice un análisis de las necesidades lingüísticas

teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de ellos este estudio deberá estar concluido antes de finalizar el presente año de forma especial el parlamento vasco insta al ente público e i te be a no establecer la obligatoriedad de conocer la lengua vasca en los puestos de trabajo de las emisoras que desarrollan sus emisiones

cosa que entendemos es perfectamente comprensible y de sentido común proponemos que este parlamento inste a la dirección general de e i te be a que en el desarrollo de su plan de euskera

accedieron a su plaza sin la exigencia del conocimiento del euskera con objetivos y plazos adaptados a las necesidades

reales de la prestación del servicio público y a la disponibilidad también económica proponemos que este parlamento inste a la dirección general de e i te be

respete las condiciones en las que accedieron a su plaza los miembros de la plantilla de e i te be y no excluya a nadie por razones lingüísticas del derecho a su desarrollo y promoción profesional y finalmente proponemos que este parlamento

el conocimiento del euskera no sea obligatorio en aquellos puestos de trabajo que desarrollan su labor exclusivamente en castellano o en los que no sea imprescindible su uso en fin nosotros entendemos que estas cuestiones son de sentido común cabría la posibilidad de en el primero de los puntos sustituir o retirar el plan de euskera dos mil trece dos mil dieciséis por

el plan de euskera dos mil trece dos mil dieciséis si el grupo estuviera de acuerdo con este cambio nosotros estaríamos encantados de corregir esta transaccional para que el grupo socialista se incluya también en esta transaccional que no tiene otro objetivo que

de los ciudadanos defender sus derechos acabar o al menos hacer frente con las exigencias

de conocimientos lingüísticos que permanentemente plantea el nacionalismo y centrarnos en lo importante y lo importante es que e i te be ofrezca un producto

e i te be deje de ser un instrumento al servicio del nacionalismo vasco lo importante es garantizar la neutralidad informativa en e i te be garantizar

e i te be no tiene ningún problema de euskara no hay ningún problema son las obsesiones de siempre

al conjunto de la sociedad nosotros optamos por defender lo razonable que e i te be sea un servicio público de calidad que haga frente a los grandes retos que tiene en la actualidad y

en los próximos años nada más y únicamente agradecer al grupo popular la firma de esta transaccional a la espera de conocer qué es exactamente lo que va a hacer el grupo socialista

muchas gracias señora presidenta señorías el grupo popular coincide con el grupo proponente con

a la dirección de e i te be a retirar o al menos a reformular la propuesta

porque se establece por la que se establece a través de este plan perfiles de euskera obligatorios que imponen

del euskera a todo el personal al servicio del ente público y de sus empresas incluso al personal que pertenezca a otras sociedades subcontratadas

añadida en esta ocasión no solo se trata de imponer la exigencia del euskera a todo el personal del ente

ahora se trata de imponérselo a cualquiera de los trabajadores de las subcontratas de la radio televisión vasca y esta exigencia se impondría como le digo a todos los trabajadores independientemente del puesto que ocupen a los trabajadores actuales y a los futuros

de la emisora en la que trabajen incluso cuando el euskera yo creo que este es el quid de la cuestión

realizar su trabajo incluso cuando la lengua de trabajo sea el castellano desde el grupo popular como en otras ocasiones creemos y se lo hemos

creemos que la dirección del ente público debe reformular

este plan lo entendemos así atendiendo al sentido común también al respeto a la libertad de los trabajadores cuando se trata como

de ámbitos ajenos a las necesidades propias de su puesto de trabajo y además también en aras a alcanzar un mayor consenso social

que en esta cuestión en este asunto también se debería

a las necesidades reales de la casa sino también trabajar en aras de alcanzar un mayor consenso

las políticas de imposición en el ámbito lingüístico lo hemos manifestado ya en muchas ocasiones creemos que es posible favorecer estamos convencidos

incremento de las relaciones en euskera y de su uso también como lengua de trabajo desde una promoción que sea respetuosa con los derechos

creemos que ese es el camino respetar los derechos de todos respetar los derechos de los trabajadores y respetar

o en las empresas pero creemos que de verdad para tratar de promover

se debe de hacer por esta vía y no a través de políticas de imposición entendemos urgente adoptar

para garantizar además que la próxima ope no suponga un ataque a esos derechos y que a nuestro juicio además no tiene sentido señora consejera aprovechando que está aquí no tiene sentido que el euskera se ha impuesto

como un requisito también para aquellos puestos de trabajo que desarrollan su labor

marginar a muchos trabajadores que hoy están viendo esa ope como una oportunidad para consolidar su puesto de trabajo

a unos trabajadores que no van a necesitar en el uso en el desempeño de su labor profesional el euskera no tiene sentido que ese esa sea una barrera

o mantener su puesto de trabajo este plan contiene dos líneas estratégicas

pero dos esa que dice que etb queda encargada de proyectar la imagen euskaldun de nuestra sociedad y ese encargo se le hace a e i te be de una manera contundente y otra que es el euskera como lengua de trabajo obligatorio de la casa las dos tratan a nuestro juicio de promover

de euskaldunización obligatorio en el ente público que no responde

ni a una demanda social ni desde luego a criterios de sentido común unas líneas estratégicas y unos objetivos porque también desarrollan objetivos que parecen contradecirse con el mantenimiento de canales y emisoras en castellano quizá ese es el debate al que debemos entrar hemos escuchado aquí cuál es la definición de normalización para normalizar se debe exigir que e i te be

quizá ese es el debate bueno pues entonces tendremos que entrar al fondo del debate

exclusivamente en euskera queremos suprimir los canales en castellano las emisoras en castellano queremos entrar al debate si sobran en este momento radio euskadi radio vitoria y etb dos si hay que

reconvertir esas emisoras y esos canales en emisoras y canales en euskera ese es el debate yo creo que con valentía el gobierno debe afrontar ese debate

desde el grupo popular a afrontar ese debate y quizá lleguemos a la conclusión aquí que e i te be debe ser una radio televisión

y entonces entenderemos como razonable que las opes y que las exigencias a los trabajadores de la casa sean

de preceptividad en la acreditación de perfil lingüístico entonces sí y nosotros no tendremos ninguna razón para venir aquí y cuestionar que a un profesional que va a tener que desempeñar su labor en castellano y exclusivamente en castellano

para poder acceder a la plaza un nivel determinado un dominio del euskera

y si afrontamos el debate con sentido común digamosoiga si vamos a una etb dos en euskera y a una radio euskadi completamente en euskera ustedes tienen razón este plan se debe llevar adelante en estos términos pero es una contradicción

mientras se está exigiendo a los trabajadores un dominio del euskera sin tener en cuenta de qué puesto de trabajo estamos hablando

primero nos dirán que sobran los trabajadores y luego nos dirán que sobran los canales quizás ese es el debate pues

lo que tenemos que hacer con valentía yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno afrontar ese debate o que bildu

y podamos debatir sobre ello en todo caso la primera consecuencia la tenemos a la vuelta de la esquina la ope prevista para el otoño de este año

ese es el horizonte en el que hoy se están fijando muchos trabajadores el euskera como condición sine qua non para poder acceder a la misma creemos que desde luego ese no es el camino por eso aprovechamos aquí para pedir al gobierno y al departamento que respete las condiciones por las que entraron los trabajadores en la casa que hoy pueden ver modificados los requisitos

no se les exigieron en su momento y que podrían suponer

defínase con claridad la necesidad real del conocimiento y el uso del euskera ese creemos que es el debate ese creemos que tiene que ser la exigencia al gobierno definir con claridad cuáles son las necesidades reales las necesidades lingüísticas reales en cada una de las plazas de e i te be eso es lo primero que tenemos que hacer

que tenemos que plantear desde aquí al gobierno definir las exigencias reales para el desempeño de las funciones de cada uno de los trabajadores de la casa de cada uno de los puestos de trabajo de la casa y actuar en consecuencia sin permitir como le decía

ningún trabajador desde luego pueda sufrir discriminación o marginación ninguna

sailburuok el problema del euskera en e i te be no es el conocimiento del mismo por parte de sus profesionales eitbn euskararen

programazioa aukeratzen y si la dirección de e i te be sitúa como uno de sus ejes estratégicos la normalización ser un agente

de lo primero que debe preocuparse es de lo que ofrece a sus ciudadanos

y esa debe ser la primera pregunta que debe hacerse la dirección de todas las ofertas en euskera de las empresas de e i te be solo la radio fórmula de euskadi gaztea si no lidera al menos está en cifras competitivas

diariamente del conflicto de los presos y de esas cosas que según el sociómetro solo interesa al dos por ciento de los vascos y que la gran apuesta de radio en euskera

la mayoría de ellos guipuzcoanos que es la tercera parte de la gran apuesta en castellano radio euskadi

es la última de las elecciones de los niños euskaldunes y vascos tiene algo que ver que ofrezca programas viejos y repetidos que simplemente no les guste y cambien de canal

y otro medio millón entiende la lengua vasca la única oferta que tienen de televisión en euskera es la menos elegida

erakunde honen pertsonalak gizarte errealitatearekin bat egiten ez duten baldintzak bete ditzan y mientras la directora siga haciendo balances autocomplacientes

del gobierno para cuadrar sus números y salvar la cara no se resolverán ninguna de las preguntas planteadas y si la dirección a la vez plantea asuntos sin buscar mínimos consensos sin garantías de cumplimiento y sembrando dudas entre los profesionales de la casa y desconfianza en otros ámbitos

de conflictos en asuntos que como la normalización lingüística creo que necesitamos abordarlo con serenidad y con consenso guk ez dugu eskatzen plana bazter dadila plan bat egotea nahi dugulako a diferencia de lo que

en su propuesta original aunque ahora en la enmienda transaccional la han reformulado y comentan de reformulación del plan ya explicaré después cómo

vemos los socialistas vascos las enmiendas transaccionales que se han propuesto en esta cámara en el día de hoy nosotros creemos que hay que analizar todos los puestos de trabajo que hay que hacer una valoración de las necesidades reales para dotarlo de objetivos alcanzables

y la colaboración de estos y por supuesto facilitar los instrumentos para llevar a cabo esos objetivos contando con la disponibilidad económica y no porque lo digamos los socialistas vascos

por parte del departamento de cultura con respecto a los perfiles lingüísticos en la administración y el sector público lo que no se puede hacer es fijar objetivos inalcanzables no se puede determinar que de aquí a dos años el noventa por ciento de la plantilla

con la evolución lingüística de la sociedad ni de ningún otro ámbito de la administración y no se puede sacar a e i te be de la realidad del país ni de las evaluaciones de los planes de normalización y lo que esas evaluaciones como decía antes ponen de manifiesto es que los perfiles se tienen que adaptar a las necesidades del desempeño del puesto de trabajo

con una plantilla que trabaje indistintamente en cualquiera de las dos lenguas y con unos objetivos de presencia del euskera que pasan por sumar

y lo decide pasando por alto los derechos laborales incluidos los de la propia promoción profesional de los trabajadores que accedieron a su plaza sin la exigencia del euskera y decide con ambición confirmada en sede parlamentaria por la propia directora y también por usted señora consejera

a lo mejor llega el día en que alguien se va a preguntar si la visualización del euskera merece el gasto de tantos canales porque ya no van a ser dos van a ser cinco

nace cojo el plan de euskera que ha aprobado la actual dirección de e i te be porque nunca ninguna dirección anterior lo aprobó nace desde un voluntarismo

y nace con el objetivo no declarado de intentar justificar un mandato basado solo en unos fines lingüísticos porque el resto de los objetivos no los van a cumplir ustedes nace con la intención de disimular la falta de ideas para diseñar un servicio público

entretenido informativo que incluya en su adaptación la adecuación al mayor conocimiento del euskera que tiene la sociedad vasca eta hauxe da erantzun beharreko galdera zuzendaritza honek euskaraz

por nuestra parte lo que demandamos en nuestra enmienda y es la que vamos a mantener un plan que profundice en la normalización lingüística en el ente que se establezcan objetivos razonables que cuente con la disposición favorable de los trabajadores que no están obligados a forzar ese aprendizaje

no vamos a firmar la enmienda transaccional con el partido popular y con upyd porque no compartimos algunas de las cosas que se dicen en dicha enmienda

se tiene que hacer la reformulación del plan sí creemos que hay que hacer un análisis de los puestos de trabajo serio y exhaustivo y para ello damos el plazo de este año

que el partido popular firme esta enmienda sobre todo en su

serias dudas jurídicas de la posibilidad de celebración de dicha ope simplemente por cumplimiento de los presupuestos generales del estado en cuya disposición adicional veinte creo recordar se prohíbe expresamente la celebración de ofertas públicas de empleo en el sector público salvo que se tenga una vinculación mercantil anterior con dicho sector público tampoco vamos

la enmienda propuesta por nacionalistas vascos y eh bildu porque creemos que no existe una voluntad real por parte de la dirección del ente

y no creemos que haya una voluntad real precisamente porque en esta misma sede parlamentaria tanto la consejera como la directora del ente así lo han afirmado

a transigir en algunas cuestiones por qué no lo manifestaron en el consejo de administración por qué no lo manifestaron en esta sede parlamentaria cuando comparecieron

sobre estos términos por lo tanto mantendremos nuestra enmienda porque creemos que hay que realizar ese análisis de las necesidades de los puestos de trabajo porque creemos que es un derecho que asiste a los trabajadores del ente para dar cumplimiento

que tengan posibilidades de liberarse para conocer

en los niveles que se les exija y también porque creemos que en la aplicación del plan estratégico aprobado por la dirección donde se habla de caminar hacia una redacción única hacia una redacción multimedia no queremos que en esa gestión que no han explicado muy bien cómo lo van a llevar a efecto y que tiene muchísimas dificultades

a firmar o conseguir apartar de su desarrollo y promoción profesional a aquellos profesionales que no dominen

debidamente por lo tanto nosotros mantenemos nuestra enmienda creemos que es lo que necesita el ente y nada más

onartu es pura pose política ustedes no quieren acuerdos ustedes no buscan acuerdos ustedes están en la confrontación en materia de e i te be y ustedes

de poca monta insisto que nosotros habíamos aceptado literalmente la enmienda a la totalidad que había presentado el partido socialista y al final que si una expresión que si una cosita que si una

nada cero pose política pura táctica política ustedes no quieren el acuerdo y allá ustedes porque nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante

de la situación de los diferentes canales y medios de e i te be en relación a los euskoparlantes sí efectivamente

qué hicieron ustedes durante tres años y medio dónde está el famoso plan en favor del impulso de etb uno que la anterior dirección había prometido

qué hicieron ustedes parece como si hubiesen no sé aterrizado

plena y eso siendo una cuestión y un problema al que evidentemente hay que abordar yo creo que mezclarlo

la verdad es que no tiene mucho sentido un ente público la radio televisión en este caso lo que no puede hacer es lo que hacen las cadenas privadas e insisto dónde está también la libertad del ciudadano a la hora de elegir un determinado canal

con qué medios cuenta e i te be en definitiva

no ha dado las verdaderas razones por las cuáles usted se ha negado la transaccional con la cual efectivamente hemos llegado a acordar con eh bildu puras excusas pura pose política

y que bueno entra dentro de la campaña que ustedes han interiorizado para ir en contra de muchas cosas y en este caso en relación a e i te be

que e i te be siendo el único ente de comunicación público que emite en euskera tiene unas responsabilidades específicas en la consecuencia de la normalización de la lengua en las actividades de promoción del euskera por lo tanto le exigimos y le pedimos que siga siendo un agente activo en este sentido y que avance que siga avanzando y luego posteriormente pues introducimos toda una serie de matices que no es más que

y que efectivamente dan bien cuenta al margen de otro tipo de consideraciones o más o menos frases hechas de lo que nosotros realmente pensamos en relación a la ope venidera y al plan de euskera en relación

otro tipo de acusaciones más o menos generales que se puedan realizar la verdad es que desde nuestro punto de vista caen en saco

situación que nosotros pretendemos cambiar y modificar no somos mayoría evidentemente pero esto no va a hacer que nos mantengamos

a todos los excesos y a todos los desvaríos del nacionalismo vasco en su conjunto esta

es sobre la política lingüística y sobre las decisiones en materia lingüística que se aplican para euskaldunizar o no y cómo al conjunto de la sociedad no es una iniciativa de personas que están a favor del euskera

es evidente que esto no puede ser así basta con observarnos todos nosotros unos a otros no es

el asunto son las políticas lingüísticas que se han venido aplicando en los últimos tiempos para facilitar la convivencia y para

lingüística señor isasi yo entiendo perfectamente los objetivos de eh bildu los comprendo perfectamente

ni gran mérito entenderlos pero los entiendo perfectamente hable además usted en castellano o lo haga en euskera los entiendo perfectísimamente y por eso

por eso los combatimos y el discurso de hb es el discurso de la imposición es el discurso de la falta de respeto es el discurso de los excesos es el discurso de las discriminaciones y efectivamente en su discurso como en otras ocasiones

sus obsesiones su carácter totalitario y su falta de respeto a los derechos lingüísticos de la sociedad vasca no nos extraña lo conocemos perfectamente mire señor isasi yo estudié porque quise

porque quise una decisión personal de hecho todavía sigo estudiándolo y hablo en euskera cuando considero necesario cuando creo que tengo que hablarlo y lo hablo por cierto a diario donde quiero y cuando quiero

en materia lingüística y cuáles son los excesos las vulneraciones de derechos incluso que se puedan producir como consecuencia de esas políticas tanto la señora mendia como el señor oyarzabal han planteado argumentos en algún caso similares a los de upyd usted está obsesionado con upyd piensa que atacamos el euskera pero es una falsedad mayúscula argumentos parecidos ha utilizado

y ha utilizado también en algún caso la señora mendia y somos tan vascos como usted no falte el respeto y son argumentos perfectamente comprensibles y razonables que tienen todo el sentido del mundo porque estamos hablando

nos negamos absolutamente y vamos a negarnos a que ustedes pretendan llevar acabo de la mano del partido nacionalista vasco de una política de imposición absolutamente inaceptable evidentemente para el partido nacionalista vasco todo aquel grupo político que ose llevarles la contraria busca la confrontación

y todo lo demás todo el que no se suma a los planteamientos del partido nacionalista vasco entra en cuestión está en peligro su vasquidad incluso

los argumentos que hemos planteado varios grupos en esta cámara son perfectamente razonables y entendibles por una gran mayoría de ciudadanos me atrevo a decir incluso por parte de algunos de sus parlamentarios me atrevo a decir eso el plan es una imposición pretende euskaldunizar al conjunto de los trabajadores de e i te be incluso a aquellos que no necesitan saber euskera para realizar perfectamente su labor esta es la cuestión y por eso pedimos

que se eche para atrás finalmente este plan

no hemos escuchado a nadie traer aquí el debate de los canales en euskera de las emisoras en euskera no seguimos hablando de que hay que mantener este plan todos coincidimos o la mayoría en que efectivamente hay que definir señor

las necesidades lingüísticas de cada puesto de trabajo que es una exigencia previa que tiene que hacer el departamento

definir claramente las necesidades de cada puesto de trabajo antes de plantear exigencias que se facilite el aprendizaje a los trabajadores

por las que entró a la radio televisión pública vasca cosas en las que coincidimos cosas que suponen reformular de alguna manera este plan y en cambio nos encontramos con que para eh bildu

eh bildu nos planteaba que para conseguir la normalización del euskera hay que euskaldunizar

completamente e i te be por qué conseguir la normalización del euskera exige euskaldunizar de manera completa e i te be

nuestras casas nuestra vida eso es normalizar eso es normalizar normalizar no era que podamos desarrollar nuestra vida

no es eso normalizar no normalizar es imponer para ustedes normalizar es imponer imponer el uso

pero si estamos de acuerdo señora mendia en cuáles son la propuestas que hay que hacer la definición de la exigencia la reformulación de algunos de los objetivos del plan no le quiero decir

lingüístico se establece el protocolo de bienvenida a los nuevos

señores que se establece un protocolo de bienvenida a los nuevos para darles a conocer que en e i te be se ha apostado por el euskera

las cartelerías las promociones de e i te be

no hay que echarles una pensada que la primera reelección se hará en euskera que los productos

se introduce la figura del tutor lingüístico se organizarán parejas

pero bueno no hay que echarle una pensada a estas cositas nosotros pensamos que sí pero el partido socialista ha decidido aquello de como la canción ni contigo ni sin ti y yo creo que esto era no sé si lo más fácil hoy pero es lo menos valiente como la canción

escuchábamos una canción por aquí detrás hace un minuto la canción de ni contigo ni sin ti hay muchas versiones yo me puedo

que decía para no sufrir ni contigo ni sin ti y decía también

aunque vuelva a tropezar ni adelante ni hacia atrás aunque

y pasar del ni contigo ni sin ti a defender con valentía los derechos de las personas

de las personas y los derechos de los trabajadores en este caso políticas lingüísticas que rechacen la imposición y que defiendan la promoción del euskera a través de los medios de comunicación

a través de las políticas de las administraciones públicas pero defender el euskera desde luego no es aplicar

es contradictorio con aplicar políticas de imposición creo que

no parece de recibo que a quien en su desarrollo profesional en el desarrollo de su puesto de trabajo de su labor profesional tiene exclusivamente que utilizar el castellano se le exija de manera preceptiva

eso sin especificar el tipo de plaza ni los canales en los que trabaja ni las emisoras y yo quiero que el pnv

y nos diga si está dispuesto a seguir con este plan que obligaría e impondría la exigencia del euskera a todos los trabajadores de radio euskadi

y especialmente que nos diga aquí si se va a mantener esa exigencia a todos los trabajadores de radio vitoria me gustaría que baje aquí y nos diga si se va a respetar o no las condiciones por las que entraron los trabajos de radio vitoria y también si se va a mantener la exigencia y se va a exigir

de radio vitoria desde luego eso contravendría aquella máxima de respetar
la realidad sociolingüística de cada territorio una vez más nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna mendia anderea zurea da hitza

por empezar señor oyarzabal la verdad es que me agrada mucho escuchar sus opiniones en representación del grupo popular sobre el plan de euskaldunazación y de normalización de e i te be que se presentó en el último consejo de administración porque lamentablemente no tuve ocasión de escuchar ni una sola palabra de boca de los que

nosotros compartimos que debe de existir un plan de normalización debe de existir un liderazgo y cuestiones que usted ponía como naifes el paisaje lingüístico

y lo que viene es un poco a marcar según los expertos una especie de liderazgo de transmisión y entra dentro de lo habitual y lo normal y en muchos otros que se hacen en el sector público y no firmamos su enmienda transaccional a pesar de que ustedes han recogido muchas de las cuestiones aportadas por nosotros

creemos que bien radio euskadi bien radio vitoria están dentro del sector público vasco y aunque sean unas emisoras que emiten eminentemente en castellano hombre algo de euskera tienen que conocer sus trabajadores y por lo tanto es por lo que nosotros exigimos es

que se les den los medios necesarios para que adquieran el conocimiento de la lengua y además tampoco compartimos ya puestos en el caso de que pudiera celebrarse porque el partido popular y el gobierno de españa así lo dicen la próxima ope de e i te be nosotros creemos que sí tiene que haber una exigencia lingüística sí

por lo tanto esas son las razones y decía el señor luke uribe etxebarria este plan se ha aprobado con consenso amplio pues hombre

del comité de empresa no lo dudo pero desde luego con los trabajadores que yo he hablado no están para nada en el consenso de este plan y la verdad es que viene a ser lamentable nuevamente que el partido nacionalista vasco resulta que cuando no estamos de acuerdo con ustedes de la a a la z habla usted de pose política cuando en realidad lo que es es una oposición propia oiga que se puede mantener o no o en este país no se pueden mantener posiciones propias siempre tenemos que estar o con unos o con otros pues no

es nuestra posición y así lo hemos venido defendiendo y lo vamos a seguir defendiendo por lo tanto de confrontación nada lo que llama la atención es que usted ha hecho una expresión muy significativa que

y de la directora del ente que es vamos a seguir adelante a toda costa nos da igual lo que ustedes digan y lo que diga este parlamento

por eso dudamos de su voluntad real y usted dice que no quieren transar con nosotros por pequeñas cositas

señor uribe etxebarria es una muestra de que lo que ustedes buscaban hoy era simplemente el aval del partido socialista de euskadi para un proyecto compartido de e i te be que tienen con los señores de eh bildu simplemente porque en el último año debo decir y usted lo sabe no han buscado en ningún momento el consenso del grupo socialista en ninguna de las cuestiones de e i te be y han hecho además gala de ello no solo en el consejo sino también en esta casa por lo tanto

porque lo que acordamos hace un año que además no es otra cosa que el cumplimiento de la legalidad vigente no lo han cumplido entonces qué razones hay hoy para hacernos creer al grupo socialista que ustedes van a cumplir con lo que hoy

y usted además quiere el aval de este grupo para la redacción única

porque se lo dijimos además a la directora en alguna reunión cuando estaba en elaboración el plan estratégico porque no se detalla no se aclara cómo se gestiona el camino hacia esa redacción única y como nos tememos que puede ser a costa de los derechos de los trabajadores es por lo que no podemos y usted que es verdad que recoge la enmienda del grupo socialista en la coletilla del primer párrafo

tercero cuarto y quinto porque habla en la línea de crear una redacción multimedia moderna y funcional y habla de la organización profesional interna

y que para mí tiene muchísimas dudas y además está siendo una gestión bastante poco transparente

ninguna razón nueva hoy para que nosotros les apoyemos por esa razón mantenemos nuestra enmienda

y lamentamos profundamente que el partido nacionalista vasco crea una vez más que cuando un grupo mantiene su propia posición es que está confrontando nada más lejos muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

lortu izan dugulako el problema señor maneiro es que para ustedes

o avance que se produzca en materia de normalización del euskera siempre les parece una obsesión discriminatoria y un auténtico abuso nosotros lo que pretendemos en este y en general con el euskera

alcanzar una sociedad multilingüe donde el euskera su conocimiento y sus posibilidades de uso efectivo se encuentre en las mismas condiciones que el resto de lenguas

en el ámbito del euskera es que pueda expresarse y pueda desenvolverse en su vida también utilizando esta lengua que no olvide es lengua propia es lengua propia de los vascos según el estatuto le puedo hablar en francés en inglés o en italiano señor maneiro o sea no me venga con esas caras

usted lo que pasa es que utiliza argumentos extremistas argumentos absolutamente radicales que es lo que le define argumentos

hablamos de redimensionar hablamos de caminar en la línea de conformar una

está por hacer pero hay que caminar hacía allí señora mendia

del ente e i te be le vengan cinco personas le parece a usted lógico no verdad no le parecerá lógico que vengan cinco personas a cubrir su rueda de prensa verdad bueno de eso estamos hablando de ese tipo de cuestiones tan prácticas normalizar usted lo ha definido señor oyarzabal es poder ambas lenguas y también por tanto existe derecho a que en el trabajo diario e interno ya sea de la administración vasca o de e i te be se pueda utilizar el euskera por qué no en estos momentos estamos en una situación contraria

no lo conoce en todo caso lo que sí está claro es que la aplicación de este plan que ha tenido una gestación larga que se inició

yo creo que detalló con muchísima precisión el calendario y

de la gestación de este plan y hubo una primera aprobación bajo la dirección del señor surio se aplicará el consentido común y con pero claramente avanzando por qué reniegan de ese trabajo hecho señora mendia

en la anterior legislatura y bajo la anterior dirección no sé si están ustedes en una deriva por la confrontación pero es lo que parece

yo no le estoy pidiendo que usted acepte lo mío de la a a la z es que precisamente yo he aceptado lo suyo de la a a la z literalmente

en la propuesta de enmienda transaccional todos sus puntos prácticamente sin tocarlos con algún añadido que lo único que venía era a reforzar

idea no se fían ni de lo que escriben ustedes dice que no se fían nosotros lo que hacemos es adherirnos a un texto que ustedes presentan y que no se fían bueno pues para eso está

grupos políticos entre los grupos parlamentarios los partidos políticos que ustedes las tienen en este caso con el ente de e i te be para pues esa función

o trabajo conjunto y colaboración para ver cómo esos pasos se van dando e insisto señor oyarzabal que nosotros en relación a alguna cuestión que usted ha planteado

nos remitimos a la literalidad de la enmienda transaccional entonces yo sí que le pido un ejercicio de seriedad de responsabilidad también

y lo aplique a la realidad alejándose de cualquier tipo de proclama que pretenda más o menos asustar o incluso rozar